jaiotze tasa igotzea y se extinguirá

o como dice el señor alonso está euskadi a la cabeza de un suicidio demográfico este es el principal problema que tiene euskadi en este momento

la verdad es que escuchando este tipo de afirmaciones parecería que hemos sufrido un tsunami y hemos perdido

y además resulta curioso que este tipo de afirmaciones catastrofistas vengan de aquellos que han creado las condiciones más antinatalistas de la historia

es que se nos acusa a nosotras muchas veces de catastrofistas pero la verdad es que tamaina handiko erronka dugu esku artean horretan

pues estas tasas de natalidad no hay más iritziak iritzi egun segurua dena itunak itun eta

orain arte planteatutakoak lo que pasa es que la euskadi del siglo veintiuno no es la antigua roma en el que el proletariado tenía una función clara que era la de procrear estamos en otro momento y desde luego las expectativas de las personas y sobre todo de las mujeres son muy diferentes

bizitza proiektuak aurrera ateratzea y el problema en este sentido es que los mayores responsables de esa precariedad están entre los firmantes de este pacto creando necesidades

orain eskuartean dugun benetako auzia es verdad que tenemos un reto de grandes dimensiones yo eso lo comparto con el lehendakari urkullu pero en eso creo

anterior con el buen vivir que con la natalidad tiene que ver con equilibrios y desequilibrios tiene que ver con romper con un sistema

tiene que ver con restablecer nuevos equilibrios entre el trabajo productivo y el reproductivo

lo que ya dejamos claro las mujeres el ocho de marzo oreka berriak ezartzea da gure eginkizun premiazkoena duintasuna eta zoriontasuna berreskuratzeko

y visto y oído lo que se dice en los últimos tiempos sobre el reto demográfico creemos que es urgente y necesario desmercantilizar las vidas y politizar la felicidad y la dignidad eso es urgente horren aurrean jakin badakigu planteatzen den egoerak

ebazpen sorta da gurea un conjunto de medidas para el buen vivir propuestas que surgen desde una perspectiva

interseccional que buscan también un pacto entre generaciones y que entienden que las políticas de familia más efectivas

buscan establecer nuevos equilibrios entre el trabajo productivo y reproductivo promueven servicios públicos referenciales empleo de calidad y un buen sistema de protección

sortzeko politikak políticas para un estado en construcción

viva justa y solidaria políticas de buen vivir políticas de sentido en un estado decente políticas

catastrofista pero desde luego en políticas de familia en relación a los problemas que tenemos de baja de natalidad de la baja tasa de natalidad envejecimiento

de estas cuestiones concretas a futuro también en la economía vasca lo que lleva es a ser absolutamente realista y después

de seis años del gobierno del señor urkullu

tenemos que decir que las políticas del gobierno

han sido poco realistas poco ambiciosas en relación a las políticas

entendemos que la política de familia tiene que dotarse de las herramientas imprescindibles para abordar de forma decidida los retos que tenemos como sociedad

tanto de forma individual como colectiva así como procurar un escenario donde las personas puedan desarrollar su proyecto de vida familia politikak

medio natural para el desarrollo de sus miembros y como la más eficaz red de apoyo solidario

e incertidumbre esan dezakegu familia

zailtasun eta zalantzako egoeretan la población de euskadi se sitúa actualmente según los datos recogidos en el anuario estadístico vasco dos mil diecisiete en dos millónes ciento setenta y uno mil ochocientos sesenta y seis personas de las cuales

y tenemos que decir que es la misma población que hace cuarenta años

pero algo o bastante más mayores este mantenimiento relativo mantenimiento de la población ha llevado sin embargo cambios en la demografía de enorme calado que tienen que ver sin duda con la caída de la natalidad de la fecundidad y con un mayor número de personas mayores

que ha llevado a la emergencia de nuevos modelos familiares a pesar de que las formas de convivencia

las relaciones de parentesco siguen siendo el elemento básico de la constitución de los hogares

las personas que viven en hogares compuestos por dos familias emparentadas ya sea a través de relaciones conyugales de filiación o de otro tipo representan el setenta y tres coma dos por ciento

y una madre representan el once por ciento del hogar de los vascos

vasca hay que decir que este índice se sitúa comparativamente no solo entre los más bajos del resto de españa sino del resto de europa y del mundo

europako baxuetarikoa dela esan dezakegu el número de nacimientos el año pasado

un tres coma dos por ciento más bajo que el año anterior según los datos también del eustat entre las madres de nacionalidad española el descenso fue del cinco coma dos por ciento

el grupo más numeroso de nacimiento corresponde a las mujeres entre treinta y treinta y cuatro años con un porcentaje del treinta y seis coma siete por ciento y hay que decir que en esta franja de edad ha experimentado un descenso de un punto porcentual respecto al año dos mil quince

en el tercer trimestre del dos mil diecisiete el número de nacimientos alcanzó la cifra de cuatro mil cuatrocientos veintidós lo que supone en ese tercer trimestre

del año anterior estos datos ponen de manifiesto los datos y las previsiones que hay a futuro que no podemos ser para nada

que entre los años dos mil dieciséis y dos mil veinticinco y según los datos del eustat va a haber una caída del veintidós por ciento en el número de nacimientos

jaitsiko da jaiotze tasa si nos fijamos el índice

es de uno coma treinta y dos muy lejos de los dos coma setenta y ocho hijos de media en el año mil novecientos setenta y cinco y de los dos coma uno necesarios para el remplazo generacional en el contexto internacional también

del país vasco se sitúa por debajo de la unión europea que es uno coma cincuenta y ocho muy alejado de países como francia uno coma noventa y seis irlanda uno coma noventa y seis

entre las causas que explican dicha disminución lejos de la simplificación que ha hecho

es decir el menor número de hijos e hijas que tienen las mujeres en este caso las mujeres vascas y si analizamos la edad media

en el año dos mil quince y se sitúa por encima de la unión europea

como italia treinta y uno coma siete irlanda treinta y uno coma seis luxemburgo treinta y uno coma cinco y grecia treinta y uno coma tres

que exige que el número de hijos medio sea de dos coma uno

en cuenta que el número de mujeres potencialmente capaces de tener descendencia se ha reducido de forma significativa también hay que tener en cuenta otro dato

importante que es el dato que nos proporciona el sociometro vasco el número sesenta y dos

y se nos dice en este número que en el año dos mil dieciséis

solo el once por ciento señaló un hijo y el cinco por ciento ninguno es decir estos datos también ponen de manifiesto que hay una brecha importante entre la fecundidad deseada y la fecundidad alcanzada el número de hijos que se tienen y el número de hijos que se desearía tener al hablar del retraso

en el momento actual como son la emancipación juvenil la construcción de proyectos de vida autónomos la edad media de los hijos emancipados

en el año mil novecientos noventa a veintinueve coma siete años en dos mil dieciséis y ya la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de la comunidad autónoma en el año dos mil doce ya nos decía y lo ponía de manifiesto la existencia de casi

que deseaban constituir un hogar y que no podían hacerlo por razones económicas también

y que va a ir en aumento los próximos años y cómo el número de personas mayores dependientes también va a aumentar de forma progresiva

el porcentaje de personas mayores de sesenta y cinco años con algún tipo de dependencia en españa representaba el veinticuatro coma cuarenta y tres por ciento en dos mil treinta será el treinta y cuatro coma treinta y dos y en dos mil cuarenta el cincuenta y nueve coma siete también en euskadi los datos nos dicen según el eustat

por cada cien menores de dieciséis años y según también las proyecciones del ine para el dos mil veintinueve en euskadi habrá

el veintinueve por ciento del total y de este porcentaje

el número de personas con más de cincuenta y cinco años rondará uno millón de personas es decir casi la mitad

estos datos sin duda ponen de manifiesto el grave problema de reemplazo generacional y los desafíos de bienestar que tenemos como sociedad datu horiek

un impacto en la economía vasca en los próximos años ya que según las conclusiones de varios estudios y de varias consultoras el país vasco tendrá un déficit de cien mil trabajadores en el horizonte años en el informe extraordinario del ararteko dos mil catorce sobre políticas de apoyo a las familias en euskadi ya se señala que en euskadi aunque la estructura familiar con hijos sigue siendo el modelo más común hay que tener en cuenta también la evolución de los modelos familiares

el incremento de la cohabitación incremento de los divorcios separaciones nulidades

familiar y la edad del primer nacimiento reducción del tamaño de las parejas y el incremento en el número y porcentaje de población infantil extranjera

con datos que creo señor lehendakari que no llaman en absoluto al optimismo

de los últimos años en euskadi según los datos del eustat

en el noventa y cinco al cero coma setenta y uno por ciento en el dos mil quince el gasto en protección social de un uno coma quince a un dos coma noventa y cuatro por ciento en el mismo periodo es decir el conjunto de las administraciones públicas vascas gastaron en el año dos mil quince un total de cuatrocientos ochenta y siete millónes de euros

en el conjunto de servicios y prestaciones económicas destinadas a la infancia y familia sin computar aquí el gasto en beneficios fiscales y el gasto en la rgi

de las últimas dos décadas se pone de manifiesto que ha habido un incremento en el gasto en las políticas de familia

ha sido muy desigual en este periodo hubo una etapa inicial de expansión del gasto entre mil novecientos noventa y siete y dos mil nueve con incrementos interanuales muy significativos y una etapa posterior desde el año dos mil diez al dos mil quince

y llegando a producirse un decremento muy significativo entre los años dos mil doce y dos mil trece hay que señalar que en el año dos mil trece

sino el peso relativo de dicho gasto sobre el conjunto del pib en la comunidad autónoma del país vasco

reduciéndose de esta forma el esfuerzo presupuestario de las administraciones vascas

revelan una cierta recuperación registran unos parámetros inferiores a dos mil doce

a la comunidad autónoma del país vasco a la situación que se daba al inicio de la década pasada y si nos comparamos con europa tanto que al señor urkullu y a este gobierno le gusta compararse con europa hay que decir que mientras en el año dos mil catorce

en la comunidad autónoma vasca se destinó un cero coma setenta y dos y en ese sentido alcanzar la media de la unión europea sería multiplicar por algo más de tres el gasto de dos mil catorce pasando de cuatrocientos ochenta y tres millónes de euros

mila seiehun milioira pasatuko ginateke en definitiva puede afirmarse que la comunidad autónoma

la diferencia con la unión europea es todavía más acusada que en las demás políticas sociales azken finean baiezta dezakegu euskal autonomia erkidegoak

en marcha por parte del gobierno vasco la ley trece barra dos mil ocho

desarrollar una política integral orientada a la mejora del bienestar y la de la calidad de las familias y de sus miembros desde una perspectiva integral

hau da ongizatearen eta familien eta bere kideen bizi kalitatearen hobekuntzara zuzendua las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos

relacionadas con el mantenimiento y cuidado de los hijos y esta ley ha sido objeto de desarrollo reglamentario para concretar algunas de las previsiones establecidas especialmente en lo que se refiere a las ayudas económicas por hijos a cargo y las ayudas

estas ayudas se configuran como un derecho subjetivo siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos y están reguladas

ciento setenta y siete barra dos mil diez de veintinueve de junio sobre ayudas para la conciliación de la vida laboral

a parte de fomentar la conciliación como un elemento de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos se incorporan las políticas de conciliación a las personas que se encuentran en una situación de extrema gravedad o dependencia

a la percepción de la población vasca de las políticas

número sesenta y dos el sesenta por ciento de la población vasca considera que las instituciones tienen la responsabilidad de fomentar la natalidad con un porcentaje que llega casi al setenta por ciento entre quienes tienen hijos e hijas menores en

según el mismo sociómetro también el ochenta y tres por ciento de la población y el ochenta y ocho por ciento de quienes están en edad de criar a sus hijos consideran que las instituciones

en este ámbito si vemos la encuesta de familias y hogares del año dos mil quince se concluye

de este gobierno son ayudas que están muy bien valoradas pero son ayudas que lamentablemente no son del todo conocidas por la población vasca

ya que entre el noventa y cinco por ciento y el cien por ciento de las personas que conocen estas ayudas las consideran

necesarias si vamos a los planes que ha desarrollado

señala que es necesario ordenar un conjunto de medidas para apoyar a las familias y en el último

de apoyo a las familias en la comunidad autónoma del país vasco se contemplaba una serie de acciones ciento sesenta y nueve acciones agrupadas en quince objetivos y cuatro líneas

actuaciones este gobierno tuvo que priorizar

y la falta de ejecución de muchas de las acciones por falta de presupuesto

hay que señalar señor lehendakari que no se ha cumplido el objetivo de convergencia con europa previsto en el propio plan que los sucesivos gobiernos han incumplido

previsiones presupuestarias establecidas en el momento inicial de la población del plan y que si vamos al gasto ejecutado en ayudas por nacimiento

de euros y el gasto en ayudas por nacimiento al final ha sido de ciento treinta y nueve millónes de euros es decir la previsión inicial era de trescientos siete coma cinco millónes de euros

en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar lo mismo el gasto previsto para todo el periodo era de doscientos cinco coma ocho millónes y solo se han ejecutado ciento treinta y seis millónes estos datos están sacados de la evaluación de los planes

en marcha hay que decir que también el plan adolecido de un sistema

útiles y para medir el impacto real de la adecuación de las políticas de apoyo a las familias y su calidad y grado de satisfacción por parte de las personas destinatarias

hay que decir que se han disminuido las cuantías económicas de los presupuestos especialmente las de conciliación en los ejercicios dos mil doce dos mil trece y dos mil catorce

desde luego nosotros entendemos que las cuestiones relativas a la conciliación no han tenido durante los años de vigencia de este plan ni la importancia ni el impulso político decidido

tenemos también que destacar que han tenido un escaso peso en este plan las cuestiones relacionadas con el ámbito educativo especialmente

todo lo que tiene que ver con horarios escolares la realización de actividad complementarias y extraescolares también ha habido una ausencia importante de medidas específicas relativas a las cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de los menores

específicas en relación con la solidaridad intergeneracional y el envejecimiento activo de la población no se han realizado convocatorias de subvenciones a las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de familia tenemos que decir

no puede ser positivo en relación a los compromisos adquiridos y a la realidad de la población vasca con uno de los índices

no solo de españa sino de toda europa con una población cada vez más envejecida y con una falta de

también evidente la realidad de este gobierno es que ustedes han aprobado

que hay que decir que llega tarde o con bastante retraso respecto a lo anunciado por el propio lehendakari

en plena campaña electoral una inversión plurianual de doscientos millónes de euros en cuatro años obviamente

de forma significativa y no hemos visto esa inversión plurianual de doscientos millónes de euros que anunciaba el lehendakari en definitiva señor lehendakari dos años de retraso y de momento no sabemos nada de esa inversión plurianual de doscientos millónes de euros que usted anunciaba en plena precampaña electoral

la realidad es que los sucesivos gobiernos han renunciado al objetivo de convergencia con europa y no se le ha dado la

para dar un impulso decidido a las políticas

que sus dos gobiernos y por lo menos este hasta la fecha ha adolecido de una clara falta de liderazgo de un firme liderazgo y una clara ambición en impulsar las políticas de familia en euskadi

no ha sido su prioridad señor lehendakari y eso que su gobierno y usted se erigió en el gobierno de las personas se presentaron como el gobierno de las personas para dar se supone solución a los problemas de las personas y poner

desde luego tenemos que decir que lamentablemente esto no ha sido así usted en sus dos gobiernos no ha abordado de forma decisiva o por lo menos este hasta la fecha de forma decisiva efectiva y realista los problemas de la caída de natalidad el envejecimiento y dependencia que presenta la sociedad vasca

y el que salgan medidas concretas pero medidas concretas efectivas que desde luego pongan solución a los problemas que tenemos depende exclusivamente de la voluntad

en la autocomplacencia o afrontar las necesidades y los retos que tenemos como sociedad nosotros hemos presentado un conjunto de propuestas que seguro que no son la panacea pero sí le digo que han sido trabajadas

y que tratan de enderezar las políticas erráticas de su gobierno

con atención en ese sentido vamos a presentar una serie de propuestas de resolución

creemos que es importante señor lehendakari un pacto vasco por la conciliación y por la igualdad que incluya a partidos políticos instituciones

y que sitúen a la política vasca en el centro de la acción política vasca a las políticas de familia e infancia creemos que tiene que presentarse

de este periodo de sesiones el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias

también tenemos que establecer una guía para las familias las que se recojan todos los recursos que se destinan a las familias vascas está todo disperso si uno accede a la normativa y a las ayudas que tienen las familias vascas tiene que recurrir a distintas páginas webs

que no nos da una radiografía exacta de la situación de las familias vascas

que impulsar todo lo que tiene que ver con las ayudas también a las familias en ese sentido hay que decir que las ayudas actualmente existentes son

absolutamente insuficientes en la línea de la convergencia con la unión europea que ustedes también se planteaban en ese plan

creemos que hay que avanzar también en apoyar

educación y en ese sentido planteamos una propuesta concreta creemos también que hay que facilitar ayudar

a los niños que tienen dificultades en la educación

bueno son muchas las propuestas que presentamos señor lehendakari pero algunas creemos que inciden de forma decidida o que intentan paliar los problemas que presentamos como comunidad autónoma en relación

a una tasa de envejecimiento muy alta a problemas con el relevo generacional a problemas con que nuestros jóvenes se van de euskadi porque no

atractiva para quedarse y eso señor lehendakari y este panorama que tenemos que desde luego no es muy optimista es el que ustedes además han reflejado en la evaluación de sus propios planes de familia yo en esta intervención me he basado en muchas de sus conclusiones

no invitan al optimismo y por eso no entendemos

no tengamos ya un nuevo plan de familia por eso señor lehendakari no entendemos que usted

y que luego esas inversiones realmente no se plasmen en los presupuestos por eso nosotros en este pleno y luego cuando debatamos y discutamos las propuestas concretas tenemos

de alguna forma la situación que tenemos y sobre todo

a los retos que tenemos como sociedad y creo señor lehendakari que usted sinceramente después de seis años prácticamente de gobierno

que las políticas de familia no han sido una prioridad y la pasada legislatura sí hubo que recortar donde primero recortó fue en las políticas de familia hubo ayudas específicas como las ayudas

a la mitad con usted como lehendakari a la cabeza por lo tanto tenemos que decirle que lamentablemente y no solo para el grupo popular sino para el conjunto de la sociedad vasca las políticas de familia no han sido una prioridad para su ejecutivo prácticamente van a hacer seis años de

y esperemos que este pleno pueda servir para enderezar en parte una política absolutamente errática

una política absolutamente sin objetivos y una política además que no está dando resultados por lo tanto espero que tengan en consideración algunas de las propuestas del partido popular que trata de enderezar la situación de las familias vascas

gracias presidenta el grupo socialista afronta este debate con el reto de hablar de igualdad y futuro porque el asunto de fondo

las que hemos desempeñado en el pasado y las que tenemos que tener en cuenta para el futuro están expresamente ligadas a las cuestiones de igualdad la igualdad de la mujer

sin limitaciones por razones económicas esta es la idea central sobre la que queremos que pivote este debate de hoy que nos propone el grupo eh bildu pero que lo hace y quiero decirlo por si acaso se pasa por alto porque el gobierno ha tomado la iniciativa y porque lo ha hecho a partir de un compromiso adquirido desde el acuerdo que suscribimos en noviembre del dos mil dieciséis los socialistas con el partido nacionalista vasco y porque este compromiso público de entonces fijó en la primavera del dos mil dieciocho aprobar el nuevo plan

habitual de las cosas y conocido este compromiso y conocido también que ese plan iba a partir de un pacto previo entre las instituciones y agentes implicados en el ámbito

se esperara a la comunicación pertinente desde el ejecutivo y se procediera a su posterior debate y mejora parlamentaria

pero no con este ahora sí bienvenido sea bienvenido porque para los socialistas era una cuestión ineludible en la agenda para esta legislatura

voy a leer literalmente lo que dice nuestro programa electoral con el que nos presentamos por última vez a unos comicios y con el que nosotros nos sentimos comprometidos las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a constituir si así lo decide libremente una familia que adquiere estructura tan diversas

los y las socialistas reconocemos la importancia de las familias como núcleos de la relación humana y de educación social afectiva y comunitaria y por ello apostamos decididamente por el desarrollo de políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares y aquellos que quiera constituir

posibles consideramos que del mismo modo que nadie está obligado a emprender un proyecto familiar

sea por razones económicas o laborales asimismo estamos convencidos de que las responsabilidades familiares que tradicionalmente han descansado sobre las mujeres deben ser compartidas

una especial atención merecen los miles de hogares monoparentales que existen en euskadi divorcio o libre ejercicio en solitario de la maternidad o paternidad la gran mayoría

especial a situaciones de pobreza por ello impulsaremos un pacto de apoyo a las familias que a través de medidas sectoriales en los ámbitos de ayudas económicas

remueva los obstáculos con los que se encuentran muchas ciudadanas y ciudadanos vascos a la hora de emprender una vida familiar o a la hora de hacer frente

contraído y respecto al pacto de apoyo a las familias se establecía

políticas públicas efectivas para la corresponsabilidad a través de medidas de sensibilización y formación

y de cuidado de hombres y mujeres y que prestigie socialmente la economía de cuidados

y mantenimiento de hijos e hijas que impulse las modificaciones normativas necesarias

homogeneizando las deducciones por realidad familiar existente en el irpf que ponga en marcha un plan de ayudas para el cuidado de menores a través de un sistema de cheque servicio desarrollado servicios profesionalizados de cuidados en el hogar

a los horarios laborales de padres y madres que desarrolle programas de apoyo extraescolar y ocio comunitario en colaboración con la administración educativa que incorpore criterios de priorización en las políticas de vivienda para las familias monoparentales y para los jóvenes que promueva la negociación colectiva las medidas de conciliación laboral y familiar y premie a las empresas que desarrollen planes de flexibilización

que la faciliten y que inste a las administraciones del estado competentes a hacer efectiva la ley de igualdad salarial y a estudiar la ampliación

o paternidad esta fue la apuesta que hicimos en el dos mil dieciséis y la que vamos a ver reflejada en este nuevo plan y en este monográfico un cambio de paradigma en las relaciones familiares que es lo que se recoge en el análisis del que parte el pacto suscrito

órgano por cierto de coordinación institucional y participación social en la ley de dos mil ocho pero que se desarrolló no por casualidad durante el mandato socialista hace dos legislaturas y décimos que es participativo porque sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado da cabida no solo a las instituciones

sino también a la representación de las distintas formas de familia que existen monomarentales numerosas de personas separadas con discapacidad inmigrantes u homoparentales y también da cabida a las opiniones de las asociaciones

no siempre ha ocurrido así no siempre todas estas organizaciones civiles han sido escuchadas para definir los objetivos de anteriores planes de familias esta vez sí

de más tenerlo en cuenta así que creemos que nadie puede obviar en esta sesión que el pacto donde están los fundamentos de nuestro plan tiene detrás un amplio

participativo y de contraste y lo que es más destacable un amplísimo consenso consenso en la evaluación del último plan en vigor consenso sobre los méritos y sobre sus lagunas y consenso sobre las cuestiones que debemos corregir todas ellas como acabamos de señalar

en nuestro plan electoral porque las consideramos muy necesarias y es hora de abordarlas

cuando estamos constatando que gran parte de las consecuencias de la crisis de la última década se traducen en forma de destrucción de empleo trabajos precarios temporalidad contratos a tiempo parcial aumento de la brecha salarial

y retroceso en la conciliación y en la corresponsabilidad y que todo ello ha afectado a las familias y especialmente a las mujeres estamos hablando por tanto de la libertad para conformar familias de la libertad para no conformarlas si no se desea

haya impedimentos para hacerlo con quien se quiere como se quiere y cuando se quiere lo que nos propone este pacto es que no circunscribamos nuestra discusión a una cuestión de ayudas al asistencialismo y al paternalismo al mero fomento de la natalidad

que veamos los riesgos que existen cuando alguien quiere tomar la decisión de formar una familia y eso le condene a la pobreza o al riesgo de exclusión que conduce a menores a la desprotección y que les conduce a heredar situaciones de desigualdades de origen de sus familias hemos construido

los derechos a la salud y a la educación sin mirar la cuestión corriente de nadie y no puede ser que la forma de protección de esos menores

y este es uno de los puntos fuertes de la reflexión que se nos plantea

y la inversión en la infancia no siendo mirado como un gasto sino como una apuesta de futuro una apuesta

es que nos hemos equivocado hasta ahora desde que la primera década de este siglo se hayan desplegado políticas públicas familiares o

toca revisar y actualizar no parece que en esta materia que ninguno de los grupos que estamos aquí tengamos que hablar de fracaso y digo ninguno aunque

y crea que las cosas puede que no vayan con ellos porque incluso en su seno hay formaciones que en el pasado han participado de esas estrategias quiero recordar por ejemplo que el plan anterior al vigente el que elaboró el consejero

tenía medidas como el aumento de ayudas por hijos y a la conciliación el aumento de plazas en las haurreskolak o el incentivo permisos de paternidad tampoco le faltaron críticas por insuficiente pero sin duda se avanzó se fue por delante de lo que se hacía en el conjunto de españa y el tercero plan el que ahora evaluamos fue más allá

se reconoce incluso a pesar de la crisis consiguió un tímido repunte en la natalidad en este que tenemos por delante se hace un balance

de esa tendencia de políticas que han sido como decía fundamentalmente asistencialistas incluso a pesar

se fijaba objetivos más ambiciosos que mi grupo considera que mantienen toda su vigencia y lo que es más preocupante aunque fuera en contra de la voluntad tanto del legislador como de los distintos gobiernos han permitido ahondar tanto en las desigualdades por género como en las desigualdades sociales

ya veníamos señalando esos déficit así lo trasladó nuestra secretaria general idoia mendia en el monográfico sobre paro y pobreza que celebramos hace tres años y medio en esta cámara donde entre otras cosas pusimos sobre la tribuna los problemas concretos a los que se enfrentan

monomarentales con mujeres sacando adelante a sus hijos en solitario y otras realidades que en algunos casos pudieran requerir ayudas pero en otros servicios públicos para tener la garantía de conciliar cuando no se cuenta mano cuestión que hemos reiterado en cada pleno de política general porque nos parece una cuestión central como quedó ya

otras políticas de natalidad de conciliación de vivienda de educación como hay para familias tradicionales porque ha costado mucho conquistar el derecho a las mujeres para tomar sus propias decisiones y no puede ser

en solitario sea un nuevo techo de cristal

un mero debate sobre ayudas para que pasara a ser un debate de derechos

mi también compañera rosa fresno apuntaba que además de cambios legislativos que no solo reclamamos sino que el partido socialista está impulsando en el congreso de los diputados

lo que está en nuestra mano por ejemplo en la administración pública vasca con medidas de flexibilidad en el trabajo en aquellos puestos en los que sea posible

fomentando el acuerdo social en la negociación colectiva para que padres y madres tengan los hijos que deseen sin temor a perder su empleo

a sus dependientes en especial a los mayores en una euskadi cada vez más envejecida debemos trabajar en evitar que los cabezas de familia monoparentales no sigan haciendo malabares para ocuparse de sus allegados en definitiva que cada cual

sin que eso le suponga un riesgo de exclusión en eso estamos en un cambio de paradigma como se señala y defiende en el pacto y para mi grupo ese cambio de paradigma pasa también por un cambio de cultura

que estamos en un debate de futuro un debate que excede de las políticas de natalidad que tienen que ver con una sociedad de iguales y con derechos y que tiene que ver con una realidad demográfica que hay que corregir a corto

y que aunque no volverá a niveles del pasado su tendencia nunca cambiaría en la medida que queremos conseguir

que consigan cambiar esas tendencias esta reflexión fue ya una cuestión estratégica en el gobierno socialista hace dos legislaturas

a todas las consecuencias de este fenómeno que está para quedarse durante bastante tiempo y que va afectar a nuestros servicios públicos al empleo y a las realidades familiares

uno de esos pilares básicos de nuestro sistema de bienestar como la estrategia sanitaria de crónicos que hoy se ha consolidado y que se mira como un ejemplo en otras comunidades como desde el ámbito público desde la administración se empezaron

el teletrabajo que se ha demostrado ser una herramienta que facilita la conciliación una experiencia que también se quiere consolidar

que ha sido una demanda reiterada de esta cámara pero compartimos también ese temor

una dualidad entre el sector público y el privado en materia de conciliación y corresponsabilidad pero eso hay que seguir legislando también en las cortes generales y tomar decisiones que garanticen la igualdad real

que ser mujer no suponga una penalización si se decide conformar

es una manera de intervenir en el sector privado porque estamos hablando de una cuestión que afecta a toda la sociedad ahora bien ni podemos

en la construcción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras eso sí debemos de propiciar esos acuerdos y desde el departamento de trabajo y justicia

la concertación de esfuerzos con los agentes sociales para que esas medidas se puedan extender a las empresas privadas es un empeño de mi partido pero es además un acuerdo unánime de este parlamento que no vamos a consentir que quede en un papel mojado

y por obligación porque no nos tomamos los mandatos parlamentarios a beneficio de inventario la brecha salarial el fraude laboral en donde se explica

de esas políticas públicas que consolidan que solo concilien ellas y por tanto un foco de desigualdad a atajar

a todos los agentes sociales a que se sienten en una mesa para proponer medidas que trasladen a la negociación colectiva y faciliten esa libertad de la que vengo hablando desde el principio

y que eso no suponga un lastre para la igualdad

del fraude en las contrataciones temporales y a tiempo parcial

de políticas voluntaristas en políticas que han sido buenas pero que están demostrando que no se tienen hijos por recibir un dinero a cambio

que no hemos conseguido revertir las bajas tasas de natalidad ni la perpetuación de la desigualdad que el modelo vigente reproduce el de siempre aquel por el cual son ellas las que se quedan en casa al cuidado de menores y mayores que les expulsa de sus carreras profesionales

parciales que les condena a la precariedad y a reducir sus ingresos que les conduce a la dependencia durante su vida laboral y al riesgo de pobreza cuando jubilar y otra cuestión que se apunta con claridad en el análisis del que parte este pacto es la dificultad de la emancipación de la juventud que es un factor directo que influye en la dificultad de conformar familias y de poder decidir si se tienen hijos en el parlamento vasco resulta que hay una mayoría de voces que piden que haya una ley integral para esta cuestión pero no puedo más que recordar

en el último segundo se echó para atrás esa opción solo porque venía de la mano de un gobierno socialista y solo por querer castigarlo en vísperas de unas

al saco de las explicaciones por las que vamos con retraso en concreto seis años a pesar

a pesar de que por primera vez se consideraba a la juventud activo de una sociedad cambiante que necesita herramientas para su desarrollo formativo laboral experiencia y adelantar la emancipación real

por eso y aunque no sea objeto concreto de debate en este pleno mi grupo parlamentario mira al plan que deberá llegar en semanas pero mira

por eso en la propuesta para la actualización de nuestro autogobierno hemos planteado que la nueva euskadi se defina en torno a la voluntad decidida de construir una comunidad en plena igualdad entre

la garantía efectiva de los derechos de estas y su reconocimiento

para el progreso de la sociedad creemos que desde el mismo preámbulo del nuevo estatuto y en su desarrollo articulado proclamemos que en el ejercicio

de la mujer se consideren las nuevas realidades familiares

en una nueva manera de conformar las relaciones económicas laborales y sociales de eso vamos a tener que seguir hablando del país en que mujeres y hombres con igualdad de derechos e igualdad de obligaciones

y unos poderes públicos obligados a garantizarlos así entendemos el autogobierno y así queremos el nuevo estatuto con derechos reales y plenos el grupo socialista tiene la firme determinación de que todo lo que afecta

a sus retos debe construirse con todos esperamos que así pueda ser en esta sesión después del consenso alcanzado en el consejo

lo que nos queda después si no conseguimos cambiar el presente nunca cambiaremos el futuro ese es nuestro reto en la estrategia

en nuestra comunidad autónoma vasca nada más y muchas gracias

es tu aldea completa con todos sus vivos y sus muertos y tu parentela no termina en los humanos también

de la respiración del bosque de las voces del viento de la furia del trueno y de la lluvia que te besa

personas que deciden cuidarse en las necesidades más básicas pero también en las emocionales

salud principios cultura apoyo económico personas que se acompañan en las alegrías y están ahí para afrontar penas y dificultades

de protección en un mundo y un modelo socioeconómico que muy a menudo genera precariedad desigualdad injusticia

especialmente de las que más cuidado necesitan de las que hoy queremos poner en el centro de las niñas niños y adolescentes de las personas adultas mayores de las personas con diversidad funcional y de todas aquellas que de forma transitoria o permanente son dependientes

y por lo tanto desde ahí enfocaremos el pleno de hoy sin obviar que esa familia obligadas a hacer el chaleco salvavidas para tantas deben asumir este papel

familias que cargan con un peso muy grande que cargan con todas las tareas imprescindibles para la reproducción social y el sostenimiento de la vida

es sinónimo de abuelas de hermanas de tías de nietas que se relevan para cuidar a las criaturas o al bisabuelo en el hospital es sinónimo de madres que deben renunciar a su carrera profesional es sinónimo de horas extras para completar salarios precarios y horas interminables que nadie paga ni valora es sinónimo de pensionistas que están poniendo el hombro cuando se prolonga el desempleo de las hijas y de los hijos

es sinónimo de mujeres jefas de hogar solas que salen adelante con mucho esfuerzo es sinónimo de jóvenes que se unen para compartir los gastos de una vivienda o de no tan jóvenes

para cumplir sus proyectos de emancipación sinónimo de familias que llegan de otras latitudes con las maletas repletas de sueños proyectos e ilusiones y encuentran un sinfín de obstáculos es sinónimo de personas que eligen vivir solas conformando familias unipersonales y son imprescindibles para el cuidado

o abuelas es sinónimo de familias compuestas por personas que también decían abrir sus casas

o a la adopción de niñas y niños nosotras hoy ponemos medidas sobre la mesa medidas para el debate y la toma en consideración porque queremos que las familias dejen de estar obligadas a cargar ese peso un peso que entendemos debe ser compartido por los poderes públicos

dejen de ser una lucha cotidiana queremos que las familias dejen de asumir todo lo que el estado está ausente queremos que el estado genere las condiciones necesarias para que las familias sean espacios para potenciar vidas digna plenas proyectos sueños

y protección queremos que esos cuidados que están en el centro de este discurso estén también en el centro de las políticas públicas y en el centro de los intereses económicos es por esto

amplia y feminizada para contribuir entre todas a la construcción de soluciones estructurales que vayan a las causas que hacen que nuestras familias

es hablar de políticas de carácter social y demográfico que desde luego y en nuestra opinión vayan mucho más allá de los pocos compromisos que este gobierno puso sobre la mesa más allá del objetivo de país

y aunque no quiero dedicar mucho tiempo a los datos sí me parece importante señalar algunas cuestiones que dejen claro a qué nos referimos las y los jóvenes presente y futuro de este país en euskadi tienen que dedicar un cincuenta y cuatro por ciento de su salario para acceder a una vivienda en propiedad

esto sobre un salario promedio según el observatorio de la juventud

con un contrato cuarenta horas semanales les quedan alrededor de cuatrocientos cincuenta euros para pagar la luz el agua los impuestos comer vestirse así difícilmente pueden plantearse ampliar el número de integrantes de su familia no creen es euskadi la que tiene una de las tasas más altas de emancipación de la unión europea con veintinueve años muy lejos de los diez primeros puestos

el sesenta y dos coma siete por ciento de las situaciones de pobreza real corresponden a cuatro tipos específicos de hogares personas extranjeras procedentes de fuera de la unión europea veintiséis coma cuatro personas mayores de cuarenta y cinco años sin ocupación estable un trece por ciento menores de cuarenta y cinco años sin ocupación estable un doce por ciento

independientemente de su composición seguido de las cuestiones relacionadas con la salud

en relación con europa la comunidad autónoma reduce muy poco la pobreza de la población infantil adolescente y sus familias y esto insisto no es nuestro sino de la evaluación

respecto a la efectividad de los sistemas de protección en la reducción de la pobreza

cómo reduce la pobreza en un ochenta y seis por ciento en los casos de personas sin menores dependientes pero baja a un veintiséis cuando hay menores

que han paliado las peores consecuencias de la pobreza sí que creemos que estos datos evidencian algo grave en nuestra opinión

te empuja a riesgo mayor de pobreza hace que tu vida sea más precaria

así que previo a la discusión sobre qué políticas creemos que tenemos que implementar para que la gente tenga más hijos deberíamos hablar de cuál es el problema de las que ya están aquí un problema que reside en la base y que tiene que ver con la desigualdad social

un problema que evidencia que las personas jóvenes no pueden emanciparse por lo tanto

un problema que evidencia que las mujeres seguimos sufriendo mayor precariedad soportando la carga de los cuidados peores pensiones mayor responsabilidad del bienestar y desarrollo de hijos e hijas seguimos teniendo peor acceso a nuestra salud sexual y reproductiva seguimos encontrando dificultades para poder vivir vidas dignas y por lo tanto

desarrollar o no proyectos de vida y ampliar o no nuestras familias un problema que evidencia que nuestras personas mayores están viviendo una precariedad sistemática desde el inicio de la crisis inicio de la crisis que hizo que se convirtieran con sus pensiones ya precarias en el sustento de muchas familias un problema que se también en que niñas niños y adolescentes sufran y consuman violencias de forma constante

en casi todos cuestiones que también dificultan y mucho

un problema en que el empleo sea cada vez más precaria garantice menos y cubra peor y por lo tanto no suponga garantizar derechos el empleo ya no da a las personas

mañana qué vamos a decir de plantearte conformar

es un problema que también afecta a quienes han tenido que marcharse de euskadi a las y a los que hemos echado

y que fuera de esta tierra han construido proyectos de vida y de familia pero no tienen posibilidades ni apoyos de ningún tipo efectivo para poder volver

un problema que también afecta a muchas familias de orígenes diversos y que a día de hoy están contribuyendo a mantener ese relevo generacional y también nuestros cuidados y se encuentran a cambio solo trabas para ejercer sus derechos en igualdad con el resto de vecinas y vecinos y que además

un problema que claramente tiene eco en el tipo de políticas de infancia que tenemos

tres conclusiones que queremos destacar la primera falta de ambición y liderazgo a la hora de impulsar políticas de familia de mayor alcance y mejor articuladas una falta de liderazgo

en el pacto y que entendemos que es intolerable y esperemos que no pase se ve también

un objetivo que pareciera que se quiere retomar con el pacto este año pero se va a abandonar de nuevo por el camino se pone en cuestión también la persistencia de una mirada de muy corto alcance que impide y cito textual el desarrollo de una verdadera política familiar en euskadi

volvemos a ver cómo aparentemente al menos repetimos errores en el planteamiento

pacto que entendemos debe de vertebrar la política pública porque es de donde se desglosará la estrategia y el plan cuestiones que queremos recordar vienen con retraso

destinar tiempo y recursos a realizar evaluaciones para desoírlas y seguir dando tropiezos con la misma piedra pero antes de entrar en el contenido voy a ir a las formas porque no me resisto

comentó nuestra compañera eukene arana en esta tribuna pero hoy tengo la oportunidad de preguntárselo directamente a usted señora artolazabal

por qué su liderazgo queda relegado a la esquinita de la foto señora artolazabal en un pacto tan central para las políticas sociales de empleo y de igualdad que usted lidera

en un acto público animaba a las mujeres a que no se autoexcluyesen y claro no podemos evitar la siguiente reflexión fue usted la que se autoexcluyó a la esquinita de la foto

las mujeres competentes y capaces en tantos ámbitos nos autoexcluimos a la esquinita

y es una pena cómo es posible que nuestras instituciones hablen y pacten sobre la natalidad

cómo es posible que su apuesta por el objetivo de país sea aumentar la natalidad y las ayudas a hijas e hijos y hacerlo insisto sin nosotras sin mujeres

que de los principios básicos recogidos en el pacto luego no exista traslado en clave de compromisos concretos esta es una señal que nos hace pensar

y ya voy a entrar al contenido del pacto porque quiero dejar claro nuestro posicionamiento respecto a las políticas de infancia que se están poniendo sobre la mesa y sobre el debate en el día de hoy en el primero de los principios básicos de este pacto se habla de reconocimiento y apoyo de la diversidad familiar

ni un compromiso concreto se realiza la mención en el primero de los compromisos y leo textual diciendo con respeto a la diversidad familiar

la diversidad de la composición de familias de su estructura de género de origen de tipología de costumbre y usos es una riqueza de eso no hay duda

en una ascensión al himalaya poder vivir esa diversidad con libertad e igualdad de oportunidades porque cuando las niñas o niños

uno o dos apartados de los formularios cuando los de las familias homomarentales deben poner madre con un boli tachando la casilla padre o quienes vienen de otras culturas o tienen un color de piel determinado

en nuestros discursos en los libros de texto o en las actividades que se realizan no estamos respetando las seguimos aislando y de esto en su pacto no hay nada

y esperemos que esto se reconduzca de cara al cuarto y que no volvamos a dejar a estas personas en la estacada las medidas concretas son

en el segundo de los principios básicos se habla de corresponsabilidad e igualdad de género y cito textual lo que dice a continuación condición

para el incremento de la fecundidad y esto pues nos enfada

para vivir vidas que merezcan la pena ser vividas para que la mitad de la población residente en euskadi no pinte menos que la otra mitad para que puedan podamos ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad

porque lo reivindica la población porque es una cuestión de derechos humanos pero no como un mecanismo de presión sobre nosotras si la apuesta por la corresponsabilidad y por la igualdad es tal tengan esto en cuenta y corrijan esto del pacto

dicho esto que es la base nos parece fundamental señalar que el único compromiso destinado a este principio

favorecer las instituciones tienen obligaciones legales tienen herramientas y tienen posibilidades para hacer más y su deber es hacer más

sin nosotras seamos corresponsables también en eso y escuchemos si no nos ponemos compromisos claros medibles y ambiciosos nos vamos a quedar exactamente donde estamos el tercero de los principios básicos sobre la combinación de servicios de atención directa y prestaciones económicas se traducen esto sí en varias medidas para las que todavía

medidas como las de favorecer los servicios de atención infantil reforzar programas de parentalidad positiva salud infantil prevención de conflictos o mediación familiar

sin compromisos concretos objetivos medibles ante lo cual no nos queda otra que desconfiar

pero cuando se entra al contenido nos damos cuenta de que ya no es universalidad lo que se persigue

contra la pobreza infantil como si hubiera señora artolazabal niñas o niños pobres en familias ricas pero además es que encontramos que las medidas concretadas en los compromisos se reducen a ninguna entendemos porque hemos querido ser empáticas y abiertas de mente

de aumentar en cuatrocientos euros al año las ayudas por segunda criatura no la vamos a criticar solo vamos a decir que de nuevo no soluciona ni aporta soluciones reales y es una medida parcial para un pacto que solo atiende a una partecita de la situación que nos toca abordar

lo que se traduce en un compromiso que pretende reorientar las políticas educativas y profundizar en la construcción de un sistema escolar inclusivo y coeducador es un compromiso necesario pero que se llevará el viento si no existe una inversión económica coherente con la importancia de la apuesta el plan de educación

cómo piensan cambiar de modelo de escuela según sus propias palabras con esta inversión económica

no se va a poder profundizar en la mejora que se persigue este principio también entronca con el compromiso

desarrollando y vuelvo a citar textual un espacio socioeducativo real a qué

o a que simplemente es una declaración de intenciones a día de hoy nosotras conocemos la labor esencial que están haciendo muchas personas fundamentalmente del tercer sector

y cuidemos nuestras palabras porque el lenguaje no es inocuo lo que es virtual en todo caso será la voluntad política que hay detrás de este principio el trabajo socioeducativo

es impecable el siguiente principio nos habla de las niñas y los niños como sujetos de derecho lo vemos de nuevo como un principio vacío no podemos verlo de otra manera

fuera instado por el ararteko a incorporar el principio de interés superior del niño y la niña la llevamos clara

respondía a esa recomendación cito textual la aplicación de este principio es sectorial

que únicamente es de aplicación en el ámbito de la infancia

procedimiento de adopción régimen de tutela y acogimiento en situaciones similares

no es relevante en esta apuesta por incorporar

esto es hacerlo sujetos de derecho no es serio no vale estar

tenemos la obligación de empezar por lo básico y lo básico es entender

son elementos que afectan a la infancia y a su correcto desarrollo a su bienestar

principio que no se reconoce en el ejercicio de las políticas cotidianas en tanto en cuanto

y solo se nombra la inversión desde una perspectiva empresarial o rentabilista y sí conocemos el paradigma de la inversión social o del estado social al que hacen referencia en el pacto pero debe ser este el foco que guíe la necesidad de invertir en familia consideran que es ético apostar por los derechos de las niñas y niños para que sean rentables en el futuro

para que se reproduzcan en un intento de sostener modelos de desarrollo voraces como los que tenemos consideran que esto es coherente con la ética y en qué se traduce

no hay ni una palabra destinada a esta inversión que dicen comprometerse a realizar en nuestra opinión los pactos de buenas intenciones están muy bien pero si no existe una concreción en los compromisos son papel mojado y ya sabemos

una base sólida para nada ni para nadie mucho menos para construir futuro coincidimos eso sí en que es fundamental abordar las políticas sociales desde una perspectiva preventiva pero insistimos como llevamos haciendo desde que hemos llegado a esta cámara

requiere inversión económica requiere evaluar el impacto de las decisiones del gobierno y no esquivar las obligaciones cuestión que de nuevo se ve reflejada en el principio que recoge el valor de la atención precoz pero no menciona

pero es que además tampoco hay ni un solo compromiso concreto en la materia

tampoco traduciéndola en ningún compromiso concreto se habla de neutralizar las diferencias y de asegurar un nivel básico de igualdad de oportunidades cómo va esto y señores hay un nivel básico de igualdad y luego uno avanzado quién tiene derecho a cada cual no les parece curioso a nosotras desde luego nos ha llamado poderosamente la atención y seguimos en este punto también sin medidas ni compromisos que se concreten en nada para nosotras la

fundamental en el conjunto de cuestiones que posibilitan o imposibilitan el ejercicio

sin una base segura para ellas sin estudios claros que son indispensables y no existen sin una apuesta seria y más allá de las buenas intenciones insistimos no vamos

poniendo parche para ir terminando esta parte los dos últimos principios carácter institucional y

y de la apuesta por invertir en familias e infancia si realmente se creen como nosotras que este pacto ha de ser lo más plural posible para ser compartido

con una versión monocromática de lo que deben ser las políticas de familia pero no solo han dejado fuera a otros partidos es que han dejado fuera también y como ya he dicho al inicio a las mujeres y no solo vista la imagen de la firma

y si realmente quieren contar con las múltiples dimensiones por qué no está presente en esto el señor azpiazu por qué hoy no está aquí la señora san josé

por si consideran ustedes que andamos desmemoriadas que ya en el mes de marzo del año dos mil dieciséis anunciaron ustedes por primera vez una inversión en familia anunciaron un gasto de doscientos millónes por año que luego no hemos visto trasladada a los presupuesto

es más cuando hablamos de inversión en familia hablamos de inversión económica también no solo pero también

el cero coma seis del presupuesto total del gobierno es esta una apuesta prioritaria porque a nosotras desde luego no nos lo parece dicho esto desde elkarrekin podemos realizamos propuestas que emplazan al gobierno a revisar el rumbo de este pacto de la estrategia y del cuarto plan que entendemos están en borrador

es de sabias y fuera de esta propuesta

una reflexión amplia y compartida con la mayor pluralidad de agentes posibles proponemos que se introduzcan otros elementos para la construcción de un pacto

de todas las vascas y los vascos de todas las vecinas y vecinos una ciudadanía que en este mes de marzo una vez más nos ha demostrado en dos ocasiones muy seguidas que es solidaria que se moviliza masivamente que es propositiva y que desea una sociedad

nuestra visión en esta materia parte de la preocupación por el crecimiento de las desigualdades en la infancia y de las dificultades económicas de las familias con hijos e hijas así como de la voluntad de eliminar los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijos e hijas deseado en lo que se refiere a la prevención de la pobreza infantil el fomento de la movilidad social y la mejora del bienestar económico de las familias con hijos e hijas

en parte al menos abordados mediante las políticas públicas de apoyo a las familias

muy diversos análisis de la incidencia y las características de la pobreza infantil en los países desarrollados ponen de manifiesto que al margen de los factores sociodemográficos que puedan existir se produce una estrecha vinculación entre este fenómeno y el diseño de las políticas sociales públicas

existe un gran consenso al reconocer el papel esencial que las políticas sociales juegan en la prevención y la contención de la pobreza infantil y en la de impulsar políticas que favorecen la igualdad de oportunidades para todas las familias

en ese sentido parece clara la relación entre gasto social público destinado a la infancia y a las familias y reducción de la pobreza infantil

y de las familias no existe sin embargo una relación directa entre políticas públicas e incremento de la natalidad los diversos análisis que se han realizado no encuentran un vínculo claro entre las diversas políticas públicas realizadas prestaciones económicas medidas de conciliación

y las tasas de natalidad y cabe pensar que existen otros condicionantes sociales perspectivas económicas configuraciones de las relaciones laborales patrones de igualdad de género etcétera que influyen en las tasas de natalidad de cada país

el aumento de la duración de la vida y el consecuente descenso histórico de la fecundidad la baja natalidad no tiene una sola causa y por lo tanto no existe una fórmula mágica para resolverla

sin embargo como antes ya he señalado sí existen razones relacionadas con la natalidad

debe reiterarse en ese sentido que la intervención pública en este ámbito no debe centrarse en las consecuencias sociales de la natalidad sino en los derechos y el bienestar de las personas

sino también a un entorno social que no facilita e incluso obstaculiza que las personas tengan la descendencia que desearían

respecto a su descendencia en este caso la actuación sobre ese entorno antinatalista supondría un intento por garantizar el bienestar

es clave por tanto que desde las políticas públicas se contribuya a la generación de un contexto social cultural y laboral que favorezca la decisión de tener hijos e hijas y o

en los de la mujer y aceptando que las fecundidades deseadas en las sociedades más avanzadas se mantienen en torno a los dos hijos

por ello a nuestro entender una de las claves de las políticas públicas a llevar a cabo se encuentra en la apuesta de las instituciones europeas por la inversión preparar

en la infancia concretada en uno evitar que se transmitan las desventajas entre generaciones lo que es una inversión crucial para el futuro de europa y por supuesto de euskadi y presenta beneficios a largo plazo para la infancia la economía

dos la intervención temprana y la prevención son esenciales para elaborar políticas más eficaces y eficientes y tres corregir las desventajas en los primeros años de vida es una forma importante de redoblar esfuerzos para abordar la pobreza y la exclusión social en general

contenidos en el pacto vasco por las familias y la infancia con la que compartimos los principios el análisis la valoración así como la propuesta de contenidos y los compromisos

son los siguientes uno el paradigma de la inversión social en los últimos años se ha ido desarrollando sobre todo en europa un enfoque que sin duda

y que trae aparejado un cambio fundamental en el papel de las políticas de apoyo a las familias otorgándoles una nueva o mayor centralidad en el conjunto de protección social

a otras orientadas a la preparación supone una nueva forma de concebir la intervención pública en relación a la infancia en la medida en que el bienestar y el óptimo desarrollo cognitivo y emocional de los niños y las niñas se considera un factor esencial de cara a la cohesión social

del conjunto de la sociedad desde ese punto de vista la inversión en la infancia el desarrollo de las políticas de apoyo a las familias la provisión de cuidados infantiles de calidad y por extensión la lucha contra la pobreza infantil se configuran como ejes básicos del llamado modelo de inversión social

las razones de la bajada de la natalidad tienen carácter estructural no coyuntural y están estrechamente vinculadas a la división sexual del trabajo a los roles de género y a la conciliación

mujeres que han recibido una educación y tienen expectativas personales y laborales que no se limitan a la maternidad

a partir de esa constatación la adopción de una perspectiva de género la búsqueda de medidas que favorezcan la igualdad de mujeres y hombres

en el marco de una organización social corresponsable son algunos de los elementos

que apuesta por un modelo de doble cuidador cuidadora y doble perceptor perceptora de ingresos en el que ambos cónyuges participan por igual en las tareas laborales o productivas

es imprescindible hacer referencia a la ampliación de los permisos de cuidado de los padres los varones

tres la intervención o la importancia de los primeros años de la vida son cada vez más numerosos y concluyentes

bajo un paradigma común que cabe englobar en el concepto genérico de los años fundamentales en el sentido de que se trata de la fase en que se colocan los fundamentos de toda la trayectoria vital posterior

tanto desde el punto de vista cognitivo como no cognitivo y que las intervenciones socioeducativas resultan tanto o más rentables o coste efectivas cuanto antes se desarrollen

en favor de la igualdad de oportunidades si se tiene en cuenta como se acaba de señalar que las bases del aprendizaje así como el origen principal de las desigualdades

todo ello no debe hacer olvidar sin embargo la importancia que tiene la intervención educativa en las etapas escolares posteriores y la necesidad de intervenir en todas fases de la trayectoria vital de las personas

cuatro las políticas de apoyo parentalidad el fomento del capital social y la coeducación

fundamentalmente por dos razones por una parte porque se corresponde con algunos de los elementos que se han apuntado previamente como la inversión social en la infancia o la importancia en las relaciones parentofiliales y de la trasmisión intrafamiliar del capital humano por otra

de las que habitualmente se analizan prestaciones económicas servicios de atención infantil medidas para la conciliación laboral y que están relacionadas con la intervención socioeducativa y la capacitación de los padres y madrea este enfoque entronca con diversas tradiciones de análisis sobre los efectos beneficios del capital social

en las que deben involucrarse no solo las familias y los agentes educativos sino toda la comunidad desde este punto de vista esta estrategia parte de la base de que los niños y niñas están expuestos y expuestas a menor riesgo si existen estructuras comunitarias

sus familias están sólidamente vinculadas con sus entornos y son asistidas por un entramado amplio de agentes del territorio cuando experimentan necesidades en este marco

de carácter socioeducativo dirigidos a toda la población infantil que tengan especialmente en cuenta las necesidades de los niños y niñas en situación de mayor desventaja

niños y niñas como sujetos de derechos e interés superior del menor de acuerdo en a lo establecido en la convención sobre los derechos del niño inversión en la infancia

es rentable y beneficia a todos la inversión en la infancia como herramienta para la mejora del bienestar de toda la sociedad igualdad de oportunidades y movilidad social reducir el peso de la herencia social en el bienestar presente y futuro de la infancia corresponsabilidad e igualdad de género

como mejor herramienta de prevención de la pobreza y de fomento de la natalidad reconocimiento y apoyo a la diversidad familiar mismo grado de reconocimiento y de protección social a todos los niños y niñas

uso combinado de servicios de atención directa y prestaciones económicas de carácter integral universalidad progresiva servicios para todos los niños y niñas compatible con la focalización del gasto y la intervención en las personas y familias con mayores necesidades la importancia del capital social y de la coeducación énfasis en la necesidad de reforzar el tejido social

y en el desarrollo de fórmulas educativas basadas en la coeducación carácter interinstitucional y multidimensional educación igualdad

garantía de ingresos cultura y políticas de salud y vinculación de agentes públicos y privados guzti honen aurrean gure proposamenak

es necesario alcanzar un consenso social y político de gran calado que permita un nuevo enfoque más centrado en el bienestar de las personas y a la vez más estratégico respecto a la infancia

los niños y las niñas las familias las empresas los sindicatos las administraciones públicas las organizaciones sociales y los partidos políticos un pacto con y para los niños y niñas con una visión consensuada a medio y largo plazo que atendiendo a las urgencias actuales apueste también por la inversión social en infancia como uno de los envites que permitirán la transformación real

dira la definición del cuarto plan de apoyo a las familias e infancia se fundamente y se basará además de las ideas que se aporten hoy en este pleno

de inversión en las familias y en la infancia ese documento comenzó a elaborarse la pasada legislatura en él han participado personas relacionadas con la administración las entidades del tercer sector y también personas expertas del mundo académico este documento de bases fue también trabajado y presentado en el consejo vasco de familia donde hay representantes de las administraciones públicas del tercer sector social del sector sindical y del mundo empresarial

de la síntesis de este documento de bases el pacto vasco de apoyo a las familias y a la infancia suscrito hace unas semanas por eudel diputaciones forales y gobierno vasco y que también conseguía el unánime apoyó del consejo vasco de la familia

compartida con administraciones y entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la familia y la infancia constituye un segundo hito en todo este proceso

este proceso culminará con la materialización del cuarto plan de apoyo a las familias y a la infancia que incluirá medidas concretas

las bajas tasas de natalidad y sobre todo la persistencia de los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número deseado de hijos e hijas y en segundo lugar las mayores dificultades económicas de las familias con hijos e hijas principales exponentes es el crecimiento de la pobreza infantil y las crecientes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades lo que cuestiona

no partimos de cero contamos desde dos mil ocho con una ley de apoyo a las familias que nos marca los principios básicos que debemos seguir en la definición de las medidas de apoyo a las familias y tenemos la experiencia de los tres planes anteriores sobre pilares firmes que nos marcan el terreno de juego así de acuerdo con la ley trece barra dos mil ocho de doce de diciembre de apoyo a las familias la política familiar de la comunidad autónoma del país vasco se basa en los siguientes valores fundamentales respeto a la libertad de decisión y elección sobre el proyecto familiar

respeto de la diversidad familiar y tratamiento igualitario

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y corresponsabilidad de ambos miembros de la pareja

como principal agente de la solidaridad intergeneracional e intrageneracional reconocimiento y respeto del papel de la familia como transmisora de los valores de libertad solidaridad respeto tolerancia e igualdad

participación y convivencia y en general los principios democráticos de convivencia social solidaridad con las familias en situaciones de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y también autonomía de sus componentes en orden a su pleno desarrollo personal dentro del ámbito familiar euskadik

además de las políticas de atención a las personas mayores las políticas de apoyo a las familias y a la infancia constituyen dos fundamentales pilares de las políticas sociales partiendo de ello reconocemos la importancia de las familias como núcleos de relación humana

apostamos por políticas que faciliten a las personas que ya tienen responsabilidades familiares y a aquellas que quieren constituir

en las mejores condiciones posibles trabajando para superar las dificultades que puedan impedirlo

ya no es la única estructura familiar en la que criarlos hay parejas que no tienen hijos y otras que los adoptan hay familias

o parejas del mismo sexo hay familias monoparentales

es decir las familias vascas de hoy en día como sucede en todas las sociedades avanzadas de nuestro entorno son más plurales más versátiles más complejas y también más frágiles uno de los motivos de esta mayor fragilidad es que existe una desigual distribución por estratos socioeconómicos en las distintas formas familiares planteándose una clara asociación entre estructura familiar desigual

reconocemos el profundo proceso de cambio en el que se encuentran inmersas las estructuras familiares

consideramos que todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social

apoyo y reconocimiento a las familias vascas de origen extranjero a las que se les añade un escalón en el camino que tienen que recorrer

en la crianza son la mejor política para el fomento de la natalidad la evidencia científica disponible demuestra que

mujeres que han recibido una educación y tienen expectativas personales y laborales que no se limitan a la maternidad

desde ese punto de vista es esencial avanzar hacia una organización social corresponsable en la línea de lo señalado en los sucesivos planes de igualdad entre mujeres y hombres desarrollados en nuestra comunidad

es imprescindible hacer referencia a la ampliación de los permisos de cuidados de los padres varones y en general a la creciente extensión de los permisos igualdad e intransferibles para ambos progenitores

vamos a promover la modificación del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez de veintinueve de junio sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral

una prestación económica para la cobertura de las excedencias por paternidad durante un periodo de doce semanas en los doce meses posteriores al nacimiento que no coincida en el tiempo con el permiso materno y con una cuantía equivalente al cien por ciento de la base de cotización se trata de una medida alternativa a lo reducidos permisos estatales de paternidad

esta medida junto con el impulso de los programas destinados a trabajar el apego la parentalidad positiva y la resiliencia

en la medida de lo posible la salida de la mujer del mundo laboral situación que se viene produciendo en la actualidad

tener unos padres más comprometidos en las tareas de cuidados supondrá ganar una batalla a la brecha salarial y dar un paso al frente en la carrera para superar las desigualdades

una legislación laboral que racionalice los horarios de trabajo y que garantice los derechos ya existentes

comprensivas tendría una influencia fundamental en este sentido asimismo

en igualdad de condiciones su carrera profesional y participar plenamente en una situación social igual para todas las personas este mismo año ya estamos desarrollando un plan piloto de conciliación

no puede establecerse una relación causal directa entre la provisión de prestaciones económicas a las familias con hijas e hijos y el incremento de la natalidad

de hecho cabe pensar que lo que las personas necesitan en vez de más dinero

es fundamental el tiempo una estructuración de los tiempos de horarios sociales acorde a sus necesidades y servicios adecuados de apoyo desde esa constatación se debe hacer hincapié en la mejora de los servicios sociales educativos sanitarios y de cuidado infantil así como la

al mismo tiempo se debe reconocer también el papel que las prestaciones económicas juegan en la reducción de la pobreza infantil y en general en la compensación de los costes que genera la crianza

para ello tendremos que reflexionar junto con las diputaciones forales sobre si la forma mixta de ayudas directas y deducciones fiscales

existen otras fórmulas que contribuyan de manera más armónica la consecución de los objetivos del nuevo plan hasta la formación de ese grupo de trabajo y la adopción de decisiones por parte del mismo vamos a seguir incidiendo en la mejora de las prestaciones económicas dirigidas a las familias con hijos e hijas de hecho se encuentra en proceso de trámite la modificación del decreto treinta barra dos mil quince de diecisiete de mayo

la ayuda a percibir por la segunda hija o hijo laugarrena

las estrategias que han tenido más éxito para abordar la pobreza han desarrollado y han demostrado ser las sustentadas en políticas destinadas a mejorar el bienestar de todas las niñas y los niños teniendo especialmente en cuenta

vulnerables efectivamente en numerosos trabajos se han puesto de manifiesto que una de las bases del éxito de los modelos de apoyo a las familias radica en su carácter universal esa universalidad no está reñida con un enfoque progresivo o focalizado que conceda cuantías más elevadas y apoyos más intensos a las familias de menor de renta o que se enfrentan a mayores dificultades

ya hemos propuesto en la reforma de la ley doce barra dos mil ocho para la garantía de ingresos e inclusión social medidas que permitan mejorar el tratamiento que se da a las

entre ellas la reducción del periodo mínimo de empadronamiento a dos años en el caso de familias con menores a cargo para la percepción de la rgi

y establecimiento de un complemento en el marco de dicha renta en el caso de personas víctimas de violencia en el ámbito familiar bosgarrena kapital sozialaren baterako hezkuntzaren eta hezkuntza ez formalera garrantzia el enfoque de reforzar el tejido social integrando sólidamente a las familias en estructuras comunitarias y apelando a estas para paliar

entronca con diversas tradiciones de análisis sobre los efectos beneficiosos del capital social asimismo se basa en la premisa de que criar y educar es una responsabilidad colectiva en las que deben involucrarse

sino toda la comunidad las niñas y los niños están expuestos a menos riesgos si existen estructuras comunitarias que velen por ellos sus familias están sólidamente vinculadas con sus entornos y si son asistidas por entramado amplio de agentes del territorio cuando experimentan necesidades

por el desarrollo de servicios y equipamientos de carácter socioeducativo dirigidos a toda la población infantil y por el desarrollo de formulas educativas basadas en la coeducación en este contexto es preciso intensificar y potenciar todas aquellas políticas de infancia y juventud que actúen no solo en clave de protección

en base a la prevención y promoción desde una concepción de la intervención socioeducativa basada en la educación y el acceso al deporte cultura y actividades de ocio y tiempo libre seigarrena

del niño de naciones unidas establece como guía básica de las políticas públicas en materia de familia e infancia

la convención exhorta a los estados a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres

sociales y culturales de niñas y niños hasta el máximo de los recursos de que dispongan que garanticen su supervivencia y desarrollo o que ayuden a los padres para favorecer un desarrollo y un nivel de vida adecuado a la infancia

a tal efecto y con el objetivo de difundir buenas prácticas evaluar las intervenciones y mantener un sistema de indicadores relacionados con el bienestar infantil y de las familias

vamos a reforzar el observatorio de familia y el observatorio de infancia y adolescencia con la siguientes actuaciones

de un comité científico asesor publicación on line de un banco de datos indicadores

e identificación y difusión de las buenas prácticas zazpigarrena haurretan inbertitzea en los últimos años se está articulando una nueva constelación de argumentos a favor de la inversión pública proactiva dirigida a la infancia

entienden que invertir en infancia supone invertir en el futuro de nuestra sociedad en este nuevo paradigma de la política social

sino que es el eje principal de una inversión social productiva orientada hacia el futuro

apoyar a las familias en dificultades para equilibrar su dedicación al trabajo y a las responsabilidades familiares o incentivar la participación en la educación preescolar de hijos de familias con bajos recursos culturales y educativos

es rentable beneficia a todos y a todas y es un elemento fundamental para la transformación de las sociedades la recomendación de la comisión europea evidencia que invertir en familia es romper el ciclo de desventajas

la población infantil corre mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general y euskadi no es ajena a ello asimismo la comisión estima que las niñas y niños que crecen en la pobreza o en la exclusión social tienen menos posibilidades que sus coetáneos

disfrutar de una buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida la prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a los padres y a las madres con un apoyo a la renta

a servicios esenciales para el futuro de los niños y de las niñas esos servicios son los relacionados con la educación preescolar de calidad la salud la vivienda y los servicios sociales así también como las oportunidades para participar y hacer valer sus derechos ayuda a los niños y niñas a aprovechar todo su potencial y les hace menos vulnerables zortzigarrena arreta goiztiarra

las investigaciones de ámbitos disciplinares dispares vinculan positivamente de la inversión en la primera infancia con una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral

una mejora en la igualdad de oportunidades entre niñas y niños de distinta procedencia socioeconómica y una mejor sintonía con las necesidades de la llamada sociedad del conocimiento

a que el momento óptimo para una intervención productiva es cuando las niñas y los niños son muy pequeños una amplia evidencia que apunta que a las intervenciones educativas

para ello profundizaremos en las políticas educativas que avanzan en un sistema escolar inclusivo y coeducador capaz de garantizar la equidad de compensar

la oferta de las haurreskolas resulta esencial en esta tarea de hecho para fomentar la adquisición de habilidades parentales para la crianza el vínculo y el apego seguro y para ofrecer a las familias apoyo en situaciones de dificultad

vasco de atención sociosanitaria impulsaremos un programa piloto de apoyo a madres gestantes jóvenes orientado

con factores de riesgo monoparentalidad riesgo de exclusión social o bajo nivel formativo

las medidas que se definirán en el cuarto plan de apoyo a las familias e infancia pretenden favorecer la movilidad social y reducir la transmisión intergeneracional de la desigualdad

reduciendo la igualdad de oportunidades y perjudicando especialmente aquellos niños y niñas que no han podido recibir de sus progenitores una suficiente dotación de capital económico

este pacto busca desarrollar políticas educativas culturales y de garantía de ingresos eso permitirá neutralizar diferencias y asegurar un nivel básico de igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de cuál sea su patrimonio económico cultural o educativo

hamargarrena erakunde arteko eta dimentsio anitzeko izaera los compromisos y líneas de actuación que se han planteado en el pacto

tienen un carácter multidimensional y afectan a diversas áreas de las políticas públicas del mismo modo

articulación competencial de la comunidad se trata de un espacio de carácter interinstitucional

y los distintos departamentos que en el seno del gobierno vasco tienen competencias en las áreas de educación igualdad salud vivienda servicios sociales cultura empleo y garantía de ingresos

resulta fundamental la implicación de todos los agentes sociales y particularmente de aquellos directamente implicados en la determinación de las relaciones laborales como son los sindicatos y las asociaciones patronales es también esencial la labor de impulso y reivindicación de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la infancia la familia y la igualdad

todo ello ha justificado la suscripción por unanimidad del pacto por las familias y por la infancia por la totalidad de las entidades

existen razones relacionadas con la natalidad que justifican una preocupación por parte de las administraciones públicas y requieren la adopción de medidas al respecto

debe reiterarse en ese sentido que la intervención pública

los niveles actuales de natalidad no responden solamente decisiones individuales o a un cambio de valores respecto a los periodos anteriores sino también

ya se ha señalado en este sentido que en parte la baja natalidad vasca puede atribuirse a una estructura social que dificulta la materialización de los deseos de las personas respecto a su descendencia en este caso la actuación sobre este entorno antinatalista supondría un intento de garantizar el bienestar y los derechos reproductivos de las generaciones en edad reproductiva es preciso

y en este sentido vamos a favorecer la emancipación juvenil y la formación de nuevas familias facilitando primeras experiencias laborales a personas con escasa o nula experiencia laboral previa para ello contamos con iniciativas como el programa lehen aukera

pero asimismo queremos favorecer la emancipación de nuestra juventud facilitando el acceso a la vivienda preferentemente en alquiler estableciendo una reserva preferente de vivienda protegida para el colectivo joven al mismo tiempo se desarrollarán nuevas fórmulas y medidas alternativas orientadas a las personas jóvenes alojamientos dotacionales pisos compartidos programas que impulsen iniciativas de convivencia intergeneracional

existen diez líneas de actuación que vienen recogidas en el pacto que yo no voy a volver a repetir euskadin

aurretik beste hiru plan egon direla cuando desde el departamento hemos asistido a la reunión interautonómica convocada por la comisionada del gobierno del estado para el reto demográfico observamos que hay comunidades autónomas del estado que hablan con orgullo de su primer plan de familia

unibertsaleko laguntza bakarrak dira a pesar del esfuerzo que las instituciones realizamos nuestras tasas de natalidad son las más bajas del estado lo que significa que una apuesta por las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas no es suficiente para que nuestra ciudadanía tenga los hijos e hijas que desean al margen de estas ayudas económicas a las familias con hijos e hijas el gobierno vasco lleva tiempo desarrollando políticas que trabajan la parentalidad positiva la mediación familiar la conciliación corresponsable y que en el próximo cuarto plan se verán reforzadas

baliabide gisa es preciso una apuesta por insistir en implantar políticas de conciliación corresponsable ya que cualquier política que quiera ser eficaz

que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

facilitando a su vez el acceso de la mujer a un empleo remunerado y de calidad y minorando la brecha salarial eliminando

medidas de conciliación en las empresas laugarren plana jarraituko du seme alabak dituzten familiei

que hacen las diferentes instituciones en euskadi ha pasado del cero coma veintidós por ciento del pib en mil novecientos noventa y cinco al cero coma setenta y uno por ciento en la actualidad

euskadi con sesenta y tres coma cinco millónes de euros es la comunidad del estado que más invierte en conciliación y ayudas a familias con hijos e hijas es la única comunidad autónoma que concede ayudas por nacimiento y adopción con criterios de universalidad y de derecho subjetivo y el presidente del comité vasco de unicef comentaba en julio que una niña o niño

podrá crecer con un nivel de bienestar infantil superior a la media europea ahora es tiempo de una estrategia más ambiciosa el principal logro de los últimos años mantener el sistema en plena crisis ello ha supuesto un paso hacia delante

y es momento de articular medidas y políticas que sirvan para que las familias vascas tengan el número deseado de hijos e hijas y que estos tengan un futuro acorde con sus expectativas

ampliación de los permisos para cuidado por parte de los padres varones

para ambos progenitores vamos a promover la modificación del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez

gradualmente una prestación económica para la cobertura de las excedencias por paternidad durante un periodo de doce semanas en los doce meses posteriores al nacimiento que no coincida en el tiempo con el permiso maternal

se trata de una medida alternativa a los reducidos permisos estatales como les decía anteriormente y que se suma a la ya anunciada por parte del gobierno vasco para los funcionarios del mismo

sobre si la actual fórmula mixta de ayudas directas y deducciones fiscales es la más apropiada para la consecución del objetivo propuesto hasta la formación de este grupo como les comentaba vamos a

de ampliar de dos a tres anualidades la ayuda a percibir por la segunda hija e hijo vamos a proponer en la reforma de la ley y ya hemos propuesto de la ley doce barra dos mil ocho de la renta de garantía de ingresos medidas que permitan

con el objetivo también de difundir las buenas prácticas y de evaluar las intervenciones y de mantener un sistema de indicadores relacionados con el bienestar infantil y con las familias vamos a potenciar el observatorio de familia y el observatorio de infancia y adolescencia

también vamos a trabajar en el consejo vasco de atención sociosanitaria que impulsará ese programa piloto para apoyo a madres gestantes jóvenes menores de veinticinco años

estamos trabajando para favorecer la emancipación juvenil y la formación de nuevas familias facilitando primeras experiencias laborales con diversos programas asimismo también queremos favorecer la emancipación de nuestra juventud facilitando el acceso a la vivienda y también

nuevas fórmulas y medidas orientadas a las personas jóvenes sobre todo destinadas a los alojamientos dotacionales pisos compartidos y programas que impulsen la iniciativa de convivencia intergeneracional nuestras familias y nuestra infancia constituyen la base del desarrollo sostenible y del avance social y solidario que euskadi desempeña en europa hoy recibiremos de este parlamento propuestas de resolución que servirán para mejorar el cuarto plan de apoyo a la familia e infancia que estamos elaborando eso sí

tenemos que proponer acciones realistas sostenibles y factibles que se tienen que ir implementando progresivamente el ejemplo lo tenemos en nuestros vecinos francia

y ahora está recogiendo sus frutos con un índice de fecundidad de uno coma noventa y siete hijos por mujer tenemos que ir cambiando

y hacia dónde queremos llegar y es para todas y todos

para este nuevo plan sea abordado con el más amplio consenso mila esker

retiren ya su reforma laboral esa sería una medida que desde luego facilitaría y protegería a muchas familias a muchísimas y además estoy segura que incrementaría solo de la felicidad la natalidad con respecto a la señora sánchez comentarlo que no entiendo esto que usted dice que nosotros hemos pedido

porque ha tenido la iniciativa el gobierno nosotras hemos pedido este debate monográfico porque hemos debatido una y otra vez antes de que se presentara este plan y hemos comentado una y otra vez

y que teníamos que ponernos mirando a otras direcciones me lo ha escuchado usted decir en muchas ocasiones no porque lo digo yo sino porque también lo dice

en ese sentido ya en ese último debate esperando a que

nosotros ya propusimos ese debate monográfico pero entendíamos que íbamos a participar de él de otra manera

nosotras hemos tomado la iniciativa porque entendíamos que era imprescindible discutir antes de que venga lo que tenga que venir tanto con el desarrollo de ese pacto

que el futuro de está estrechamente ligado a las políticas de igualdad nosotras lo compartimos

pero me gustaría que me explicara cómo se hace eso cómo se compagina eso con políticas que ponen en el centro la natalidad

fundamental de la natalidad eso para mí es un problema fundamental y usted hablaba

hablaba de consensos del consenso que giraba en torno a ese pacto y se lo digo también a la señora artolazabal es verdad que hay un alto consenso que los agentes mostraron ese consenso amplio con este plan pero también hay un consenso muy amplio en otra cosa y es en decirles que este plan se quedará en meras palabras este pacto se quedará en meras palabras

de presupuestos y usted sí el plan y el pacto porque un pacto que luego no se desarrollen medidas pues me explicará usted para qué sirve

que una inversión en el futuro de los niños una inversión en la protección

que es una buena política de inversión social desde ese paradigma que tampoco es nada nuevo pero que ustedes ahora traen con motivo de este pacto y después

es tan buena inversión como es la inversión en familias en general es que una inversión en políticas de protección es una muy buena inversión es una inversión

ampliando ese foco no solamente a los niños y a las niñas sino también a los padres a las madres a las personas que conviven con esos niños y con esas niñas y a otras personas que no conviven con niños y niñas y que han elegido otras formas de vida porque parece que aquí se va a crear un mantra

de que las mejores políticas de protección son las políticas de natalidad una cosa que

no se puede aceptar o es que para que tengamos mejor nivel de protección vamos a tener que formar parte de familias de familias además que sean muy clásicas pues no

de contradicciones las tenemos que aclarar porque además el pacto se dirige

en otra dirección yo creo que son las personas las que deberían estar en el centro y cuando las personas están en el centro pues también

y todo tipo de cosas y hay una cosa que no puedo compartir

y que esas traerán felicidad buen vivir y seguramente también un incremento de la natalidad es

muy claro no y usted ha hablado también ha mencionado usted

porque usted hablaba que las medidas concretas llegarán con el plan pero ha mencionado algunas ha mencionado la reforma de la rgi bueno ha mencionado una serie de medidas un poco que quieren

sin embargo el dato que yo he dado antes de solamente tres de las familias que perciben la rgi salen de la pobreza creo que nos lleva

a las cuantías que se debería de abordar o incluso de cómo

la responsabilidad colectiva en la crianza no puedo estar más de acuerdo pero ustedes no quieren desarrollar una de las herramientas que tendríamos para esa responsabilidad colectiva de la crianza que es la ley de servicios sociales y se están haciendo las remolonas con el desarrollo

reforzar el observatorio de la infancia se refuerza con recursos

ha mencionado aquí que quieren hacer que el observatorio de la infancia lleve adelante son funciones ya por decreto de ese observatorio eta nik uste dut

mahai gaineratu ditugu para nosotros este pacto de familias debería ser la base que nos permitiera establecer un pacto social un pacto de amplio consenso una especie de red de red de protección de red de igualdad y una red de dignidad tiene que ser como esas líneas de vida a las que se suben los alpinistas que les permite afrontar

retos y las aventuras más osadas pues eso debería ser eso debería ser deberíamos crear un gran pacto social en torno a la dignidad de las personas eso es lo que necesita este país no más natalidad que vengan los que tengan que venir

pero que los que vengan puedan vivir bien puedan disfrutar puedan ser felices y los apoyemos en

sailburua mire señora kortajarena a veces cuando hablamos de estos temas

pensamos desde el grupo popular que no estamos en unas posiciones tan diferentes pero luego usted siempre

hace algunas afirmaciones que hace que llegue a pensar que efectivamente las diferencias

y a ustedes que les gusta tanto mirarse en el espejo de europa las ayudas en europa son universales ayudas universales

países que desde luego nosotros los tenemos como espejo y entiendo que ustedes también porque su referencia

de la unión europea ayudas absolutamente universales y las cuantías fíjese no solo en algunos de ellos hasta los dieciocho años sino hasta los veintiuno años por lo tanto

es que si en los países avanzados que están a la par con españa en políticas de familia hacen unas políticas de familia y de ayudas a las familias que están dando resultado pues yo creo

señora kortajarena que es un buen espejo en el que nos tenemos que mirar porque esas políticas están dando resultados fíjese alemania fíjese dinamarca fíjese

están dando resultado y por lo tanto es en el espejo en el que sin duda se mire el partido popular claro usted me habla de los incrementos nosotros hemos incrementado las ayudas por natalidad y las ayudas por la conciliación unas en tres millónes de euros y las otras en dos coma cinco

usted me dirá cuál es la solución es que los países que ya hace tiempo vieron que el problema de la natalidad era uno de los principales de la baja natalidad era uno de los principales

se fijaron en las ayudas a las familias a las ayudas por nacimiento en las ayudas por conciliación y nos sacan muchísimo y nosotros a través de propuestas concretas que llevamos planteando ya hace tiempo encima de la mesa y hoy volvemos a plantear una más

en relación a esta cuestión queremos una convergencia con europa porque parece que es la línea

que tenemos en europa y es que estamos en una de las sociedades con las más bajas tasas de natalidad no solo de españa sino del resto de europa y del resto del mundo y creo que eso es para hacérselo mirar y para que este ejecutivo liderado por el señor urkullu

hubiera tomado medidas y cartas en el asunto mire tenemos una de las bajas natalidades más bajas no solo del resto de españa sino del mundo los jóvenes se nos van y por otra parte esas ayudas que parecen que eran útiles y así lo entendía el gobierno en el tercero plan de familia la convergencia con europa en las ayudas

pues no hemos llegado es que la convergencia con europa era para el dos mil veinte

es incrementar las ayudas por nacimiento en el segundo hijo o sea no tenemos ni vemos ambición en este gobierno para

que este gobierno está instalado en la más absoluta autocomplacencia en estos temas que este gobierno

no está poniendo las políticas de familia en el primer lugar de su agenda política y a los hechos me remito el tercero plan de familia

estamos en el año dos mil diecisiete y no tenemos un nuevo plan de familia

tenemos aquí una estrategia vasca de familia e infancia aprobada pero es un marco tan general

medidas concretas y específicas que solucionen y palien los problemas que tenemos como sociedad vasca de las tasas de natalidad más bajas no solo de europa

los jóvenes se nos van dígannos qué sociedad vamos a tener en el futuro

somos los mismos que hace treinta años solo que bastante más viejos algunos más otros menos pero somos los mismos tenemos un problema como sociedad en el reto demográfico y en las políticas demográficas que hay que hacérselo mirar y creo que este gobierno está absolutamente instalado en la autocomplacencia y en la absoluta inacción en las políticas de familia y cuando

no lo ha hecho hay que decir que este gobierno ha recortado las ayudas a las familias hay que decirlo

no ha sido poner en el centro de sus políticas las políticas de familia recortando las ayudas a las familias precisamente los incrementos que han venido en los presupuestos en esta legislatura han venido de la mano del partido popular

las ayudas tanto por nacimiento como por conciliación y en la línea de la convergencia con los países de la unión europea y en la línea con los propios objetivos que nosotros nos marcamos

ambiciosos que tenemos que ser realistas y que este gobierno debería de haber afrontado un problema de primera magnitud que tenemos como sociedad y no lo ha hecho ha seguido instalado en la autocomplacencia y desde luego no ha puesto las políticas de familia en el lugar

es que las ayudas por nacimiento o por hijo a cargo luxemburgo doscientos dieciséis euros bélgica ciento doce euros alemania ciento ochenta y cuatro euros

desde luego con carácter universal es decir que es para planteárselo por qué la tendencia en europa es establecer ayudas en carácter universal en la inmensa mayoría de los países de la unión europea

en algunos de los países hasta los dieciocho años y en otros hasta los veintiuno años creo sinceramente que tenemos que mirarnos en el espejo de europa

han sabido detectar los problemas y han sabido anticiparse y poner en marcha políticas realmente efectivas y realmente que sirvan para subsanar los problemas que tenemos

es que estamos en el año dos mil diecisiete y no tenemos un plan de familia señora consejera no tenemos el principal instrumento

las medidas concretas que son necesarias para revertir una situación que creo que es absolutamente problemática voy a ceñirme en las propuestas partido popular algunas no son nuevas pero desde luego comprobamos una vez más falta de decisión compromiso

en este gobierno en el diseño y una política fundamental como es las políticas de familia y para paliar todas esas deficiencias que

y volvemos a plantear un pacto vasco por la igualdad y por la conciliación pero que incluya a los partidos políticos no que se quede en el ámbito institucional no que incluya a todos los partidos políticos

en el centro de la acción política vasca el reto demográfico y las políticas de familia en infancia y a la hora de elaborar este cuarto plan de familia que llega con absoluto retraso

ya acabó su vigencia en el año dos mil quince queremos líneas estratégicas medidas concretas consignaciones económicas concretas y sistemas de evaluaciones a la mitad y al final para ver el grado de cumplimiento de las medidas

que sean de calidad y queremos que igual que tenemos una herramienta que es medir el impacto de género podamos mirar el impacto familiar en las normativas elaboradas por el gobierno vasco

para que conozcan los recursos que tienen en el seno de la comunidad autónoma del país vasco desde las distintas instituciones una guía absolutamente

mire una de nuestras principales propuestas y en línea con la convergencia con europa ese objetivo que ustedes ya tenían previsto hace unos años pero que se lo han dejado por el camino proponemos un cheque fiscal vinculada a la declaración de la renta independientemente de su resultado

por cada hijo menor de dieciocho años que conviva con el contribuyente estas son medidas realistas estas son medidas

a revertir la situación que tenemos en la comunidad autónoma del país vasco y estas son las medidas que miran realmente a lo que se está haciendo más en los países más avanzados de europa

ya que a este gobierno tanto le gusta mirarse en el espejo de europa que se mire en el espejo de europa

están dando resultado y estas son las políticas que están dando resultado proponemos por eso un importe una ayuda fiscal un cheque fiscal en la declaración de la renta

contribuyente proponemos también ya sabemos que es competencia de las diputaciones forales pero que

planteamos también avanzar en la gratuidad del primer ciclo de educación infantil concertado en el tramo de dos a tres años y avanzar en la eliminación progresiva de las cuotas en el tramo de cero a dos años hasta alcanzar la gratuidad total para dicha etapa del sistema educativo también planteamos iniciativas extraescolares

conciliar la vida familiar laboral y personal también programas específicos que se puedan realizar en el ámbito educativo para inculcar la importancia de la conciliación responsable y parentalidad positiva y también proponemos crear

hay que también fomentar que las empresas que están instaladas en nuestra comunidad autónoma también fomenten medidas en favor de la conciliación o potenciar el portal concilia que sea una herramienta efectiva de apoyo y acompañamiento a las empresas o promover el teletrabajo en el sector privado

en la corresponsabilidad en el valor de la familia en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres estas son las propuestas

pero creo que son propuestas que van en la línea del espejo de lo que se está haciendo en los países de la unión europea y son las políticas que realmente están dando resultado y son realmente las políticas
que han permitido amaitzen joan mesedez si me lo permiten revertir el problema de natalidad

claramente a la cabeza en las cifras con las tasas de natalidad

algunas de las soluciones modestamente están es estas propuestas espero que las miren con atención

bueno señora kortajarena le he indicado en mi primera intervención

que precisamente nosotros dábamos por bienvenido

pero que era evidente que se habían venido realizando diferentes cosas con anterioridad como eran

posible y participación también el acuerdo en el pacto para las familias y que ya estaba prevista dentro del programa sí perdona te estaba buscando no sabía dónde estabas

que ya recogíamos dentro de nuestro pacto de gobierno entre el pnv y el psoe pues bueno cosas ya se han venido haciendo recientemente hemos vivido una reacción de la sociedad este ocho de marzo donde se ha visto que se producía una mayor concienciación de la necesidad de avanzar en la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres y tenemos que conseguir en nuestra políticas públicas que esta concienciación no se quede movilización un ocho de marzo sino en un antes y un después claro en la lucha por la igualdad la señora ha dicho que debíamos de avanzar en medidas que eviten desigualdades desde la infancia nosotros hemos dicho que estábamos de acuerdo

no solamente a las familias tradicionales si me ha escuchado bien en mi primera intervención yo he hecho clara referencia a esa situación

nos ha hecho referencia en su intervención a la necesidad de llevar a cabo un conjunto de políticas que dé respuesta a dos fenómenos que han visto que son de carácter estructural como la baja tasa de natalidad derivada de otras causas de persistencia de obstáculos que dificultan a las personas que puedan desarrollar su proyecto familiar y tener los hijos que deseen

a un crecimiento en la pobreza infantil así como crecientes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades lo que pone en cuestión el principio de igualdad de oportunidades

ha constatado no solo lo señalado anteriormente sino también pese a los esfuerzos realizados en los últimos años que las políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas tienen

como ocurre también en los demás países del sur de europa un margen de mejora importante al menos si se comparan con las que se desarrollan en otros países de europa y hoy tenemos en este pleno una oportunidad para seguir trabajando en esta mejora ya he señalado en mi primera intervención que estamos ante un cambio de paradigma la principal característica de este nuevo paradigma es el cambio de énfasis desde unas políticas orientadas a la reparación y

a partir de la consideración de políticas de familias educativas y de igualdad de género entre otras como un elemento clave y fundamental para el desarrollo no solo social

en servicios que permiten invertir en la infancia generar las condiciones que permiten un cierto nivel de igualdad de oportunidades y de movilidad social

y transición a la edad adulta apoyar a las familias con hijos e hijas y facilitar el acceso a las mujeres al empleo remunerado de calidad pero es muy importante que la natalidad no se valore solo en términos

en función de sus implicaciones individuales ya que afecta a la satisfacción vital de los individuos y a su propio bienestar eso es

en mi primera intervención por eso es importante que el objetivo último de la política de familia que queremos que salga de este monográfico y de las medidas

no sea solamente el de aumentar el número de hijos e hijas que tienen las familias sino

reproductivas de quien las conforman la realidad actual es que las familias no están teniendo el número de hijos e hijas que desean por unas dificultades que encuentran por tener el tiempo necesario para poder conciliar la vida personal y laboral y por la baja corresponsabilidad en cuidados de hijos y de los mayores entre otras

los datos más recientes sobre pobreza encubierta que ofrece la encuesta de pobreza y desigualdad social apuntan a la existencia de un contingente

un nuevo hogar y que no pueden hacerlo por razones económicas los problemas asociados a la falta de empleo adecuado o a la inestabilidad en el trabajo destacan la baja de los salarios en general después de la reforma laboral del dos mil doce y los bajos salarios en particular

junto a las dificultades que pueden tener para emanciparse y acceder a una vivienda son los principales obstáculos que dificultan el proceso de emancipación además

han interrumpido en los últimos tres años su actividad laboral por problemas

la consecuencia de esta realidad actual es el riesgo claro de pobreza en las familias con hijos a su cargo más de treinta mil personas viven

uno de esos efectos más importantes que tiene el incremento de la pobreza y la desigualdad en la infancia tiene que ver con unas menores posibilidades de movilidad social

en la sociedad del conocimiento las oportunidades vitales de las personas

y cognitivo acumulado desde los primeros años de vida

de exclusión provienen y lo harán en mayor medida en el futuro si no hacemos políticas que cambien de forma efectiva

de la diferente capacidad de las familias y los sistemas educativos para ofrecer en esos primeros años de vida los estímulos y aprendizajes necesarios

en este contexto euskadi se sitúa en la cabeza del estado en la escolarización en el primer ciclo de educación

nórdicos pero tenemos que seguir dando pasos en ese sentido el principal problema que tenemos

que está mucho menos orientado que el de los demás países de la unión europea a la infancia y a la familia con hijos e hijas por lo que tenemos que corregir

situación numerosos trabajos han puesto de manifiesto que una de las bases del éxito de los modelos de apoyo a las familias radica en su carácter universal pero tal universalidad en todo caso no está reñida como un enfoque progresivo que conceda cuantías más elevadas y apoyos específicos

de menor renta es claro que contamos además con un sistema vasco de garantía de ingresos que evita que reduzca las tasas de pobreza real dentro de la población de un treinta y seis por ciento pero estas rentas son solo una parte de nuestro sistema pero que debe de completarse desde luego con unas políticas de familia que sirvan a largo plazo para cambiar esas tendencias mi grupo parlamentario está de acuerdo

porque la igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad en la crianza política para el fomento de la natalidad

las actuaciones que se deriven de este pacto habrán de hacer hincapié en la mejora de los servicios sociales educativos sanitarios y de cuidado infantil

en el marco de una conciliación corresponsable cuando el pp nos hablaba de la responsabilidad de los diferentes

gobiernos yo entiendo también que se debe y se tienen que referir también a la responsabilidad de medidas que se han adoptado también

que estoy de acuerdo con la señora kortajarena que han incidido de forma clara crecimiento de las desigualdades que afectan directamente

y a la infancia y también de las que se han tomado desde diferentes diputaciones hoy en este monográfico tenemos la oportunidad de seguir trabajando en esta línea y de buscar el más amplio consenso político en las políticas públicas que han de tomarse para conseguir este objetivo nos toca ahora
trabajar en ello nada más y muchas gracias eskerrik asko

a ver si consigo ordenar todas las ideas lo primero que quiero traer a esta

sorprende profundamente que estemos teniendo como una suerte de dos debates paralelos unas hablamos claramente de políticas de infancia y familia otras hablan de políticas

hablar de políticas de inversión en familia es tener esa capacidad de mirada amplia tal vez este monográfico es el inicio

para pensar para hablar para acordar en mediación lo primero que se hace es establecer un lenguaje y un glosario común de término una definición

y eso una definición clara de objetivos de lo que estamos persiguiendo cuando venimos aquí a construir estos discursos hace parte de construir el bien común y

y la reproducción social no la reproducción de las personas a parte de esto sí me gustaría también traer otra reflexión que me surge de una expresión que ha dicho la señora sánchez pero que en cierta medida hemos reproducido unas más que otras pero hemos reproducido todas formar familias es sinónimo de tener hijas o hijos eso

lógico y consecuente de la educación recibida que la tenemos todas

pero claro si estamos hablando de políticas de inversión en la infancia y familia tendremos que hablar de infancia y tendremos que hablar de familia y tendremos que hablar de esas niñas y niños

como sujetos de derecho sujetos de derecho que necesitan un entorno familiar

reduccionista al enfoque del problema que estamos abordando hoy corremos el riesgo de poner sobre la mesa soluciones que parcelen y que no vayan a encontrar todo lo que vayan a abarcar

curiosidad una curiosidad que me surge cuando de repente todas las personas que

se apuntan a ser punta de lanza en torno

los derechos de las mujeres yo se lo recuerdo digo se lo recordaré cuando vuelvan a venir los presupuestos y se lo recordaremos todas las veces que estamos

si hay un compromiso serio con la igualdad tiene que haber un compromiso serio que tenga su correlación en los presupuestos verdad recuerdo por ejemplo en noviembre de dos mil diecisiete cómo traemos a esta cámara una iniciativa para aumentar el presupuesto

machistas y la igualdad a la que ustedes votan en contra y llegan por contra a un acuerdo que no habla

ahí cada cual cómo se cuelgue la medalla sabrá qué es lo que tiene dentro hablamos de

en falta que seamos capaces de transversalizar a todo el gobierno no solo a su departamento señora artolazabal

save the children viene proponiéndonos sistemáticamente apostar por planes para la prevención de la violencia que no le corresponderían

pero que tampoco se quedan en tierra de nadie y que tampoco parece que le importen

señor urrutia ha hablado usted del decreto de cartera y de la importancia de la intervención socioeducativa cuestión que también ha mencionado la consejera lo decía en mi discurso inicial en el pacto se habla de que a partir de ahora sí que vamos a hacer una apuesta real

yo quedo a la espera de que se les dote de recursos suficientes porque esa inversión real esa necesidad de apostar y poner en el centro de la intervenciones socioeducativas si no se dota de recursos no va a ninguna parte más que a la precariedad de quienes están jugando

en trabajos en los que no tienen los recursos necesarios para conseguir los objetivos señora artolazabal gracias por nombrar hoy a las personas migrantes

aprovechamos para recordarle que son nuestras leyes la ley de vivienda la ley de servicios sociales el decreto regulador de etxebide las que establecen la obligación

a las que estamos dejando fuera se lo recuerdo hoy veintiuno de marzo y se lo recordaré el resto

me va a salir como por las orejas cuando hablamos de pobreza infantil en lugar de hablar de infantilización de la pobreza estamos parcelando un problema

está demostrado que hay personas que tienen hijas e hijos por lo tanto son familias que también cobran la renta de garantía de ingresos usted ha hablado de proponer medidas que vengan a mejorar

que están teniendo que compartir viviendas en euskadi no por gusto sino por necesidad sí de esas no se acuerda no se acuerda tampoco de que la rgi solo acaba

se lo repito yo ahora necesitamos soluciones estructurales a problemas estructurales

parece que tienen la voluntad asuman su responsabilidad y sean serias propongan compromisos concretos no puede usted venir aquí a decir que va a fortalecer el observatorio de la infancia y lo va a reforzar con más tareas teniendo a una persona trabajando

se vayan a ampliar esos recursos ya lo siento señora artolazabal me parece que su compromiso

son inconcretos son pobres y me parece que se dejan fuera a la gente dónde quedan las personas con diversidad funcional en el pacto por la inversión

no tienen hijas e hijos acaso las personas con diversidad funcional no tienen derecho a tenerlas a que se las tenga en cuanta como sujetos de la política pública también

no puede ser gracias por dejarnos aportar en cualquier caso con este monográfico al plan

no tiene nada que decir también le quiero mencionar una última cosa ha hablado del aumento de la natalidad en francia gracias a políticas de inversión en infancia y familia no lo dudo pero se está olvidando usted de nombrar

muy directa con las personas migrantes y refugiadas que viven en francia y que son francesas de segunda generación y que están contribuyendo igual que aquí a aumentar la natalidad y a proporcionar relevo generacional ha dicho también

los niveles de protección son de los más altos de europa pero se ha olvidado de decir que cuando tienes menos de dieciocho años también tienes unos de los riesgos más altos de caer en la pobreza cuando hablamos de universalidad y no damos toda la parte y tenemos en cuenta todas las personas estamos desdibujando el concepto nosotras entendemos que el consenso

todas las partes no solo unas pocas entendemos que habría que reformular algunas cosas y habría que escuchar

de las que se han escuchado hasta ahora entendemos que hay que invertir en la gente porque eso es importante y en eso coincidimos con la política que ustedes nos traen aquí al menos sobre el papel

el principio del bienestar y de la garantía de derechos para las personas tiene que ser lo que oriente todo esto no puede ser la rentabilidad social o política señora garrido voy acortando qué entienden ustedes por universalidad porque la verdad es que me quedo bastante sorprendida cuando lo repite creo que han sido nueve o diez veces pero luego

pasa a un segundo plano en el universo del pp parece que no estén las pensionistas precarias ni los jóvenes ni las personas a las que su partido ha dejado sin seguridad social no están las migrantes ni las refugiadas no sé así desde luego

dicho esto repito nosotras apostamos porque este pacto contribuya a que entre todas seamos capaces de luchar por una sociedad más justa más solidaria más igualitaria y más participativa para todas las personas y para que todas seamos libres

eta da esaten nuenean debe reiterarse que en este sentido que la intervención pública en este ámbito no debe centrarse en las consecuencias sociales de la natalidad sino en el derecho y en el bienestar de las personas eta

las mejores políticas de protección son las de familias

alderantzizkoa esaten ari garela nosotros lo que realmente queremos es fomentar unas

que también lleven a tener a quien así lo desee los hijos

atacando básicamente ese parámetro que se llama el déficit del bienestar que es precisamente esa relación entre los hijos que uno o una quiere tener y los que

que ha querido impulsar usted hasta ahora nosotros estimamos que este plan es

pero esto tampoco sucederá de la noche a la mañana la ambición de este plan si me permite y no me llame autocomplaciente por ello

al menos es poder convertirnos en un país nórdico del sur de europa y esa es la ambición

los datos que usted ha aportado del diferencial que tenemos con países como francia suecia y o alemania

aunque bien es cierto como he dicho en mi primera intervención que esto no se resuelve solamente con políticas públicas

el balance de las dos últimas décadas la evolución del gasto los incrementos interanuales un repaso de las políticas de familia hasta ahora no que no señora garrido en este momento nuestra intención al menos es mirar hacia delante no hacia atrás y el reto en este caso es enorme y se necesita de todas y de todos y también de ustedes por eso yo

que haga virar su discurso en algún punto con respecto a la señora guanche

no es cierto que aquí algunos estén hablando o por lo menos no es cierto yo no lo veo como cierto que algunos estén hablando de políticas de infancia

otros de políticas de natalidad yo creo que al menos nosotros estamos hablando en las políticas de

de políticas de natalidad y tal y como he dicho que nuestra intención es básicamente atacando este déficit del bienestar poder también hacer crecer la natalidad pues sí es cierto pero esto en un ámbito muy centrado de las políticas de infancia y de familia que como largamente

creo que transversalmente toca muchos ámbitos

la palabra esto es de tomarnos un tiempo para ir conjugando nuestros lenguajes

me parece algo importante y mire para terminar

la foto le dan mucha importancia a la foto del pacto bien

mire yo le voy a hacer una reflexión qué es lo que yo veo en la foto

tres veces representados al cien por ciento de los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca uno en la figura del lehendakari dos en la figura de los tres diputados generales

que representa a doscientos cincuenta y uno municipios de euskadi y

si hubiese cinco mujeres en esa foto yo vería lo mismo porque la representación social

sí los votos y los votos articulados en las instituciones

de esos niveles institucionales por lo tanto

a nivel de anécdota no es lo más importante yo me quedo y ya le digo y le repito

para ir conjugando lenguajes eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna